votarán esta transaccional los dos grupos que han

votarán a favor de esta transaccional los dos grupos que han acordado esta

del portavoz socialista explicándome que habían ustedes llegado a esa transaccional pues bien

esa transaccional porque además en nuestro caso como después explicaré

transaccional si no recuerdo mal creo que al propio portavoz del grupo socialista le expliqué qué era lo que nosotros no compartíamos de esa transaccional bueno no recibí tampoco

del consenso y del acuerdo pues pueda explicarme el portavoz socialista cada uno de los puntos de la transaccional que ustedes han firmado este es un tema

desde la primera vez que alguien habló en este parlamento de esta cuestión treinta años el año mil novecientos ochenta y cuatro ya se hablaba de esta cuestión en este parlamento treinta años después como consecuencia del entramado institucional

y como consecuencia de las excusas en forma de problemas técnicos que distintos gobiernos han planteado y por aquello de la incapacidad de muchos gobiernos de

competencias a un gobierno superior o evitar dar la razón a otros gobiernos pues estamos como estamos treinta años después seguimos hablando de lo mismo lo cierto es que en el año dos mil diez aquí se

se pactó se acordó una transaccional votada por todos los grupos por el partido nacionalista vasco partido socialista de euskadi partido popular aralar ezker batua

en el año dos mil diez se proponía instar al gobierno vasco a presentar para el año dos mil once un plan de actuación para la implantación de la tarjeta única de pago

de la cav se instaba al gobierno a que el mencionado plan detalle los plazos para la implantación del billete único las asignaciones presupuestarias

por un mayor uso de transporte público así como los pasos a seguir para lograr una integración tarifaria y se instaba al gobierno vasco a que estudiara las posibilidades de ampliación de lo recogido en el plan de implantación de la tarjeta única en los viajes que se realizaran mediante transporte público

de upyd todos estábamos de acuerdo en esta cuestión cuatro años después

hay algún avance en algún territorio pero lo cierto es que seguimos sin tener esa tarjeta única que nosotros también defendemos ya digo que en aquel debate el señor maeztu que militaba entonces en las filas de aralar

hablaba de la necesidad de implantar una especie de tarjeta única ya en el año mil novecientos ochenta y cuatro es decir llevamos treinta años hablando

cuatro años qué es lo que pasa para que no se puedan poner los mimbres encima de la mesa y poder acordar entre todas las instituciones instauración de una tarjeta única nosotros seguimos defendiendo tarjeta única que es lo que hemos recogido en nuestra enmienda de totalidad que será la que nosotros en todo caso votemos cuáles son nuestros principios efectivamente

única de transporte no varias tarjetas compatibles no varias tarjetas correspondientes a cada uno de los territorios

no una tarjeta única autonómica digamos en este caso para el conjunto de euskadi que pueda utilizarse en cualquier medio de transporte de la cav

incluya bonificaciones o descuentos para aquellas personas que más la usen y para aquellos colectivos más desfavorecidos y obviamente aquí habría que tener y sería fundamental tenerlo en cuenta el nivel de renta de los usuarios digamos que estos son

y esto es lo que nosotros defendemos y es lo que hemos querido plasmar en nuestra enmienda de totalidad y es lo que nos habría gustado poder pactar con algún grupo de la cámara

acordar estos principios defenderlos para que se puedan poner en marcha cuanto antes evidentemente

treinta años después habría que superar las reticencias políticas que siguen existiendo en euskadi por aquello de las luchas territoriales

y superar también los problemas existentes como consecuencia del entramado institucional que padecemos

lo de menos habría que superar los problemas técnicos que pudiera haber habido en el pasado que puedan existir ahora o que se puedan plantear en el futuro pero

para el conjunto de euskadi que se pueda utilizar en cualquier medio de transporte y que recoja bonificaciones para aquellas personas que más la utilicen

desfavorecidos yo no sé si esto en concreto lo compartimos o no una mayoría de grupos no lo sé porque hay veces que no sé si por

no se puede hablar con algunos grupos en relación a estas cuestiones se me explique en todo caso en el turno de réplica por parte de los distintos grupos si compartimos esto

bastante razonable y ahora me centro en la transaccional pactada entre el grupo socialista y el grupo eh bildu compartimos el primer punto

y el tercer punto en relación al tercer punto y en relación a los objetivos que se plantea que esta tarjeta única deba tener compartimos el primero de los puntos

es decir que el mismo recorrido tenga el mismo coste sea cual sea el medio de transporte que se utilice sea cual sea el operador que proporciona el servicio nosotros no lo vemos no nos parece razonable igual

pero no lo vemos que pueda tener el mismo precio el mismo trayecto independientemente del medio de transporte utilizado no lo entendemos ni sabemos ustedes plantean esto y creo que además en este punto digamos que compartimos los planteamientos del partido nacionalista vasco por lo que hemos podido hablar con el grupo nacionalistas vascos

y en relación al tercer punto último compartimos la primera parte del mismo que tenga una tarifa unificada es decir que la tarifa sea la misma en los distintos medios de transporte

una política concreta de descuentos a los usuarios basada en su nivel de renta y en la frecuencia de uso para que los que menos tienen tengan acceso al transporte

el transporte público en fin espero haberme explicado esta es nuestra posición estos son los principios que defendemos esto es lo que creo que debería haberse hecho ya

por el entramado institucional y por problemas informáticos quizás pero creo que esto es lo que debería hacerse y ya digo en relación a esa transaccional que ustedes han firmado

no compartimos otros por lo tanto votaríamos nuestra enmienda de totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari señora consejera las administraciones públicas hemos asumido que debemos de realizar actuaciones en favor de la movilidad sostenible por la preocupación que tenemos por la problemática medioambiental y sociales que hemos ocasionado por la generación

en el uso del coche particular las políticas para potenciar una movilidad sostenible deben contemplar varios objetivos el primero configurar un modelo de transporte más eficiente

tres incrementar la calidad de vida de los ciudadanos cuatro

en los desplazamientos cualquier actuación que pretenda lograr esos objetivos es buena como por ejemplo la creación de un billete único en el transporte público de euskadi

no puede ser simplemente una tarjeta inteligente que permita viajar en los distintos operadores de transportes del país vasco no solo

como pretende que sea el gobierno vasco para el partido socialista el billete único además de una tarjeta recargable para poder pagar el uso del transporte debe conllevar

los de renfe y cercanías debe servir para la ampliación de las mismas tarifas en todo euskadi a partir de las zonas

del medio de transporte utilizado de origen y llegada debe suponer un instrumento para la bonificación a los colectivos merecedores de mayor protección como los jóvenes y estudiantes los desempleados las personas con riesgo de exclusión social

usan el transporte y los que menos ingresos tengan deben además fomentar la coordinación y potenciación adecuada de la oferta de los distintos modos de transporte

para todos los ciudadanos si elaboramos un billete único cumpliendo con estas premisas es la forma que lograremos de verdad fomentar una estrategia de movilidad sostenible

por los ciudadanos desde un punto de vista funcional y operativo el billete único es el que permite integrar a distintos operadores en un mismo soporte de pago

y ya nos lo dijo la consejera de medio ambiente en una comisión de control al gobierno pero para nosotros esa condición no es suficiente

y para ello se necesita una gran colaboración institucional con el billete único que plantea el gobierno vasco

pero nada más porque no aplicará las mismas tarifas en esos modos de transporte

los usuarios conozcamos cuál va a ser el coste del viaje a realizar independientemente

independientemente del transporte que utilicemos esto es lo que pedimos los socialistas vascos

con lo que el gobierno vasco denomina billete único ya que con ese billete único lo único que lograremos los vascos es pagar con la misma tarjeta

y no podrán servir los viajes realizados en los distintos medios para tenerlos en cuenta a la hora de bonificarse por el uso del transporte público

se sentaron las bases para que el billete único se haga una realidad

están trabajando en un documento de definición del proyecto que permitirá que los alaveses con la bat

puedan pagar en cualquiera de los transportes de euskadi pero señorías eso no es suficiente

con importes diferentes según el transporte que se utilice y fomentar una competencia directa entre los diversos operadores

un principio un billete único que contemple también una integración tarifaria donde paguen menos los que menos ingresos tengan

habituales del transporte público eso es lo que solicitamos señor maneiro con la enmienda transaccional que ha firmado eh bildu y el partido socialista y es por lo que solicitamos el apoyo y si quiere que le responda dentro de los principios que usted plantea

no entiendo por qué no va a dar su voto favorable a ese punto

en cuanto al punto de la tarjeta única el gobierno no plantea crear una tarjeta única sino plantea que con las tres tarjetas se puedan pagar en los tres territorios

comparte y sí comparte con nuestro posicionamiento y en relación a los puntos dos y tres que hace referencia a que el coste por ejemplo sea igual en todos los tramos que se realicen

pero a lo mejor el coste del metro es mucho más caro y el precio

tenga que asumir el irse hasta una parada mucho más lejana de su vivienda para coger un transporte determinado por lo tanto

a la ciudadanía el que pueda utilizar el transporte que desea y que el coste del billete no sea ningún impedimento por lo tanto eso es lo que planteamos que independientemente del transporte que quiera realizar la gente independientemente de

una tarjeta única que puedan pagar menos en función de los usos que hagan y menos en función de las rentas que tengan muchas gracias

la interoperabilidad es un requisito indispensable para poder hacer realidad la tarjeta única y tanto para conseguirla como para avanzar en una mayor integración tarifaria

porque partimos de realidades diferentes por un lado la realidad organizativa y funcional de cada territorio es diferente las políticas tarifarias seguidas en cada territorio también son diferentes

sino que además los operadores son diferentes y de todo eso tiene constancia el partido socialista porque encargó

un estudio de interoperabilidad de tarjetas y títulos de transporte de euskadi finalmente este estudio fue realizado por y que durante

en el gobierno vasco no llegaron a acuerdos y no pusieron en marcha por qué porque todos sabemos que hay muchas dificultades y que la base de todo va a ser el acuerdo

hablamos de quién compensa y cómo la diferencia del billete ocasional a precio monedero que está siempre subvencionado hablamos de las diferentes tarifas en relación a la edad

hablamos de la diferente consideración de colectivos descuentos de bonos hablamos de acordar sobre los diferentes tipos de tarjetas

hablamos de la necesidad de estar empadronado o no hablamos no solo de interoperabilidad por lo tanto lo que queremos dejar claro

por un lado nos extraña que el partido socialista haya pactado con euskal herria bildu y haya entrado en esa estrategia política de imponer o querer imponer un modelo determinado a diferentes territorios y también señalar tal y como ha dicho el representante de upyd que nosotros tampoco compartimos

que proporciona el servicio porque no todos los modos de transporte tienen los mismos costes y por lo tanto los estimamos que no podemos repercutirlos de la misma de la misma manera como tampoco lo hace eh bildu desde la diputación donde gobierna cuando los seis kilómetros que separan donostia de pasaia valen lo mismo que los doce kilómetros que separan urnieta de donostia

gracias presidenta buenos días señorías lehendakari consejeros consejeras en este caso

en el año dos mil diez que no iba a ser fácil porque la verdad es que en euskadi tenemos una realidad

pero entonces ya también fijaban nuestra posición la posición de nuestro grupo posición de apoyo e impulso a la creación del billete único se hacía necesario caminar en esa dirección no solo para impulsar el transporte sino como él decía para facilitar la vida a la gente y es verdad que

dado el marco competencial de las instituciones que intervienen en esta cuestión estado comunidad autónoma

ya que cada uno de ellos presta unos determinados servicios con diferentes tipos de transporte

también existe una decidida apuesta por ordenar la coordinación en materia de transporte además de otras funciones mediante la creación de órganos singulares constituidos bajo la denominación de autoridad del transporte eso sí configurados con distinta naturaleza jurídica

la pluralidad de las administraciones que intervienen en la materia con competencias en distinto nivel y

dificulta y es una cuestión a tener en cuenta

un sistema integral de transporte en euskadi concebido como una red a la que acceda la ciudadanía decidiendo de manera completa y coherente información

sobre la situación actual del sistema de transporte en el territorio histórico de bizkaia señorías como todos sabemos también tenemos en la comunidad autónoma la autoridad de transporte en euskadi creada por ley cinco barra dos mil tres es un órgano colegiado de la administración general de la cav

planificación coordinación hasta inspección y consulta órgano en cuyo seno existe ya una ponencia para trabajar en la hoja de ruta

ya se ha mencionado día veinte de marzo celebrará un pleno siendo el billete único

y dicho esto que es poner el marco a día de hoy paso a tratar la propuesta que hoy nos trae a debatir propuesta que como ya he mencionado

hace treinta años decía el señor maneiro como ha hecho referencia y fue también objeto de explicaciones más recientemente de la señora consejera en junio de dos mil trece tarjeta única para álava

pues evidentemente es uno de los retos principales de esta legislatura y en el que ya se están dando avances no al ritmo que quizá sea deseable

muy complejo sabemos que los tres territorios con sus competencias están trabajando en esa línea porque tenemos tres sistemas distintos

y tienen su ámbito en cada uno de los territorios y que por tanto la implantación del billete único en la implantación del billete único la colaboración institucional es absolutamente

que en el seno de la autoridad de transportes se creo esta ponencia especifica y sabemos que se está trabajando

bat barik todos tienen segunda fase en interoperatividad en gipuzkoa bat barik

y evidente que la implantación del billete único en euskadi fomentará el transporte público

desde una perspectiva de la movilidad sostenible y nuestro grupo como ya lo hizo en el dos mil diez

apoyará que la autoridad de transporte coordine

competentes con las diputaciones forales y a las entidades estatales competentes en la materia y continúe trabajando para contar con una tarjeta única para álava y gipuzkoa que pueda utilizarse para pagar los viajes que se realicen en cualquier territorio municipio medio de transporte u operador así

para que con respeto a las competencias se aplique una eficaz y equitativa política de bonificaciones

nada más que mostrar mi sorpresa en que este parlamento se camina hacia atrás por que si ya en el dos mil diez como también se ha dicho pero quiero recalcar si en el dos mil diez este parlamento todo el arco parlamentario

marcar unas distancias conviene coger en algún territorio algunas banderas nada más y muchas gracias

en los sistemas tarifarios unificados del transporte de cada uno de los territorios históricos considerando su nivel de ingresos edad y situación laboral

hasta la puesta en marcha de la tarjeta única alegia orduan bai errenta aintzat hartu behar zen

sí gracias presidenta no tenemos ningún problema en salir a la calle tantas veces como sea necesario para explicar cuáles son

votamos en contra o nos abstenemos en función de las materias y en función efectivamente en algún caso de quién plantee esa propuesta o de quien firme la transaccional

desde el principio de la legislatura ojalá tuviéramos más oportunidades en los medios de comunicación para explicar sin ningún tipo de problemas cuáles son nuestras ideas nuestras propuestas y por qué votamos una cosa o la contraria no tenemos ningún problema lo llevamos explicando toda la legislatura

y creo que los diferentes grupos conocen cuáles son nuestros principios en este caso concreto compartimos con la transaccional firmada por eh bildu y el partido socialista el fomento del transporte público compartimos que el transporte sea sostenible compartimos también la idea que tienen de tarjeta única

entre sí sino una tarjeta única autonómica para el conjunto de euskadi y en este punto insistimos en que la distribución competencial no debería ser

objetivo compartido no sé si por la mayoría de grupos pero sí por algunos grupos de esta cámara y compartimos también que existan bonificaciones para los que más

con menos recursos donde efectivamente debería tener gran importancia el nivel de renta obviamente o si la persona usuaria tiene trabajo o no y compartimos también escuchados los argumentos de los que han firmado la transaccional que la propuesta del gobierno vasco se queda corta efectivamente compartimos todo eso seguimos sin ver lo del mismo precio para el mismo trayecto independientemente del medio de transporte utilizado no lo vemos

no vemos su sentido no sabemos por qué no lo entendemos por lo tanto no podemos votar a favor de esa transaccional tampoco votaríamos a favor de esa transaccional porque está firmada por eh bildu y nuestro voto sería decisivo en ese caso como ustedes saben perfectamente nos abstenemos pero no compartimos el hecho de que un mismo trayecto valga lo mismo independientemente de si uno utiliza el autobús el tren

en alguna ciudad vasca no lo vemos nos parece absurdo no tiene sentido nos parece más razonable dar la posibilidad de elegir pagar algo más para ir en un medio de transporte en lugar de en otro nos parece esto lo más razonable es nuestra postura y efectivamente

cuando nuestro voto es decisivo no votamos a favor de enmiendas transaccionales firmadas por eh bildu cuando nuestro voto es decisivo lo sabe el parlamento y ojalá lo sepa el conjunto de la ciudadanía

a los que no vamos a renunciar mientras el grupo eh bildu no condene a eta esto es más importante que el transporte público por lo tanto seguiremos defendiendo nuestras propuestas seguiremos defendiendo el diálogo con los partidos políticos democráticos pero no vamos a dialogar con eh bildu usted me pregunta usted que sonríe y se ríe tanto y yo le respondo

se sabe cuál es la posición de upyd es una cuestión de principios democráticos los principios democráticos están por encima de cualquier otra cuestión vamos a ser

vamos a defender esta postura siempre mientras eta no se disuelva

o mientras ustedes no condenen a eta y exijan su desaparición definitiva e incondicional en fin se lo explico para que usted me oiga lo entienda

el resto de grupos que creo que lo entienden perfectamente y lo sepa también el lehendakari la consejera la otra consejera que está enfrente mío y el conjunto de los ciudadanos estamos muy orgullosos de no votar enmiendas de transacción firmadas por eh bildu cuando nuestro voto es decisivo me pregunta

la señora iturmendi han hecho referencia a que hace treinta años se debatió este tema

en el dos mil diez también se debatió la señora iturmendi ha dicho que caminamos hacia atrás

otro año que es el dos mil ocho que también se debatió sobre este tema

en relación a una moción consecuencia de interpelación que presentó el partido socialista en relación a la accesibilidad de la juventud en el transporte público se consiguió el consenso unánime de toda la cámara

en la cámara pero el resto de sesenta parlamentarios que estaban sesenta votaron

el pp se acordará el señor matute porque intervino en el debate

intervino en el debate y usted también se acordará y la señora vaquero

votaron a favor de crear un bono único para jóvenes de treinta años en función de las rentas familiares usted votó hace poco tiempo también una pnl del partido socialista para establecer unos bonos sociales en función de la renta

por lo tanto qué es lo que sucede que por el dos mil ocho ustedes sí votaron a favor tanto la señora vaquero como usted

porque entonces eran jóvenes y estudiantes y ahora es todo la ciudadanía vasca esa es la diferencia claro

que yo he visto los vídeos señora iturmendi y que está igual que hace seis años que estaba sentada al lado del señor sémper

igual igual igual de joven y de todo entonces qué es lo que sucede

parece razonable que si apostamos por el transporte público desde aquí también intentemos facilitarles en la medida de nuestras posibilidades que no son pocas

señorías hagámoslo por eso proponemos esa enmienda transaccional a través de los cuales facilitaremos a todos los vascos y vascas poder pagar

de sus ingresos y en función de los usos que se hagan

de las dificultades que tiene la gestión de una tarjeta única como la que pide el partido socialista

y se lo digo como lo siento euskal herria

que no es posible que el gobierno vasco entre los distintos medios de transporte de gipuzkoa como un elefante en una cacharrería eta barkatu

del dos mil diez y aunque diga usted que estoy parecida pues la enmienda sí que es

mostrar el acuerdo en lo básico y nos hemos alejado de ese acuerdo de lo básico

en que a alguien le interesa dividir y a alguien le interesa que esta cámara

a la autoridad de transporte que haya un reflejo de una falta de unanimidad

unánime desde mi punto de vista para caminar en esa hoja de ruta tan necesaria pero hoy se me escapa debe de haber otras cuestiones para esa división

no sé si tanto en el fondo como en la forma porque evidentemente claro que estamos a favor de las bonificaciones claro que estamos a favor de los bonos sociales

pero no estamos de acuerdo en que el mismo recorrido tenga el mismo coste por mencionar algunos puntos

pormenorizar concretar especificar será un paso más que haya que hacer en esta hoja de ruta pero hoy toca lo que toca hoy deberíamos estar unidos como lo estuvimos

y bien es verdad que la composición de este parlamento ha cambiado igual es por eso

a acuerdos en esta materia tan sensible y de la que se está haciendo bandera insisto se está o se va a estar haciendo hoy a la tarde reitero se reúne la autoridad de transporte que es el órgano que tiene que coordinar sería deseable señorías que en esta cámara mantuviéramos una postura y ambición de país naturalmente que la tenemos muchas gracias

los socialistas nos vemos en la obligación y en la necesidad de defender lo público al servicio de los intereses de las mayorías

que promociona en españa el gobierno de la derecha y lo vamos a hacer el mismo día en este parlamento

que se ha sustanciado este asunto y nosotros hemos defendido la misma postura

privada ha pasado su último trámite parlamentario antes de verse publicada en el boe pensamos que esto supone una vuelta de tuerca más del gobierno de españa en su cruzada por la restricción del estado de bienestar de los servicios básicos
que debe prestar a la ciudadanía isiltasuna mesedez estamos hablando

eliminando prestaciones sociales o introduciendo recortes drásticos de gastos en educación y sanidad con la intención nada disimulada de irlos privatizando algo que en materia sanitaria ha estado a punto de ocurrir en madrid y no ha ocurrido

de movilizaciones ciudadanas y de la intervención judicial que ha recordado muy oportunamente que el estado de derecho guarda también relación con los derechos sociales de los ciudadanos le ha tocado el turno a la seguridad y con el mismo esquema el mismo gobierno que impone serias restricciones a la contratación pública en los sectores de la seguridad del estado

con una clara deriva privatizadora e involucionista que lejos de atenuarse se ha visto acentuada en toda su tramitación parlamentaria lo acaba de comprobar

inexplicable votó a favor del texto legal a su paso por el congreso con la esperanza según dijo de introducir mejoras a su paso por el senado

que le obligó a cambiar en la cámara alta su voto afirmativo por la abstención ante la evidencia de que el gobierno de rajoy no estaba dispuesto a cambios sustanciales en su ley además pudo comprobar perfectamente como la mayoría absoluta del pp

esto le ha obligado a votar en contra de todas las incorporaciones que el pp hizo en el senado es decir ha cambiado su postura inicial cuando votó afirmativamente al proyecto de ley en el congreso de modo que tanto el pnv como su gobierno han acabado compartiendo los temores que desde el principio manteníamos los socialistas

que tal y como había quedado en el congreso el proyecto además de no garantizar las competencias de euskadi en materia de seguridad ni ofrecía garantías suficientes ni dejaba clara la preeminencia de lo público ni la capacidad de los vigilantes jurados para efectuar detenciones esperaba que todo eso quedará despejado en el senado pero no ha sido así

queda por eso muy lejos el optimismo exhibido en su día por el grupo nacionalista cuando defendió públicamente

una ley que no nace tal como se justifica de una

fruto de los cambios sociales ni nace tampoco de una necesidad que la sociedad no siente

tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de europa lo que persigue esta ley

con la cobertura jurídica necesaria al negocio integral de la seguridad del estado

que permita ir traspasando la seguridad del estado a manos privadas es verdad que la ley no deja de expresar un buen número de reconocimiento a la preeminencia de la seguridad pública

más explicaciones no pedidas que otra cosa porque lo cierto es que esta ley no es como afirma el gobierno del pp una simple actualización de la anterior es por el contrario un texto legal

que hasta la fecha estaban exclusivamente en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado consagra una progresiva deriva privatizadora de la seguridad pública

porque pasa de subordinar la seguridad privada a la pública como consagraba de manera nítida la todavía vigente ley de mil novecientos noventa y dos a considerar ahora la seguridad privada como auxiliar o complementaria de la seguridad pública y complementario señorías según el diccionario de la lengua española quiere decir algo que a otra cosa en este caso esta cosa es la seguridad ciudadana lo dice desde la propia exposición de motivos cuando afirma que la ley pasa de poner el acento

el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan como son de cooperación o corresponsabilidad y ahonda en el principio de subsidiariedad este es como digo esto es un texto leído extraído de

y la segunda innovación de la ley según su exposición de motivos es menos control de la seguridad pública sobre la privada textualmente también se dice en esa exposición de motivos que los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada

para la seguridad pública desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública desregulación

esto es lo que todavía el proyecto de ley quiere ir introduciendo en la seguridad pública a través de formulas de cooperación público privada que amplíen y hagan irreversibles los ámbitos susceptibles de ser abordados desde la seguridad privada y bajo este eufemismo el de la colaboración público privada

a los servicios públicos y a las propias administraciones públicas favoreciendo a su vez por las políticas a su vez las políticas de deterioro constante de la seguridad del estado puestas en marcha por el gobierno de la derecha este proyecto de ley es gravemente lesivo para el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía porque el interés general representado por los servicios y servidores públicos queda transferido a empresas privadas con intereses particulares que giran en torno a la obtención de beneficios privados

en españa queda mucho campo para la seguridad privada y dijo campo pero podía haber dicho negocio que es lo que en realidad estaba pensando y nos aboca

aquellos afortunados que por su situación económica se la puedan pagar porque esta ley es una ley de seguridad para los ricos

de seguridad ciudadana que el gobierno de la derecha está preparando aunque con notables dificultades en la que criminaliza la protesta social la que va intentar recortar las libertades la que intenta

y todo esto en un país en el que las manifestaciones violentas representaron tan solo el cero coma uno por ciento del total

el pasado año según datos aportados además por el propio gobierno pero al parecer ese cero coma uno por ciento es ya demasiado para el gobierno de rajoy

para contener a una mayoría social con el fin de perpetuar el orden y la seguridad de los que pagan porque al gobierno de rajoy la constitución y las garantías y controles constitucionales empiezan a venirles un poquito grandes empezó atetando contra los derechos sociales de los ciudadanos

libertades y sus derechos públicos empezó recortando las políticas de bienestar y ahora está recortando la democracia

del país y nos vuelve a descubrir a santa teresa velando por españa

solo ha sido capaz de encontrar una respuesta para atajar el malestar social que sus políticas han creado la represión una represión todo hay que decirlo muy selectiva

no se enteró a su debido tiempo que el hijo de tejero conmemora

era el máximo responsable estaba al parecer tan ocupado en controlar los desórdenes de la calle que fue incapaz de detectar el desorden grave de exaltación del golpismo cuando se produce en dependencias bajo su mando y algo tenemos que decir todos nosotros con respecto a esta cuestión que afecta seriamente a la calidad de nuestra vida democrática

la máxima institución representativa de un país que ostenta competencias en materia de seguridad este parlamento

es que las políticas de seguridad tienen que seguir estando en manos de los poderes públicos y que por eso mismo rechazamos de plano cualquier intento privatizador en este ámbito por que atenta contra las libertades y los derechos de la ciudadanía en su conjunto queríamos instar al gobierno de españa a retirar la ley es evidente que hemos llegado tarde el rodillo de la mayoría social ya hoy ha puesto este proyecto de ley en camino al boletín oficial del estado pero en cualquier caso creemos que es importante que este parlamento se defina y nos manifestemos sobre esta ley

como va a ser nuestra propuesta y por supuesto también instamos en nuestra proposición al gobierno vasco a defender abiertamente en todos los ámbitos el carácter público de las políticas de seguridad a que ponga en este empeño

en otros no es coherente desde nuestro punto de vista que estén reclamando desde el gobierno vasco la reducción de los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y titubeen como lo han hecho en este caso ante una ley que consagra el reparto de la

entre lo público y lo privado y bendice el negocio de las empresas privadas a cuenta de la seguridad de las personas pero en cualquier caso y aunque haya sido en el tiempo de descuento congratulamos del cambio de postura del partido nacionalista vasco que ha permitido algo que para nosotros es importante como es la posibilidad de haber firmado una enmienda transaccional

y por parte de esta cámara al proyecto de la ley de seguridad privada

habíamos planteado una enmienda de totalidad para complementarla o quizás

pero en todo caso ya digo que los argumentos planteados por el señor unzalu y su iniciativa original pues van en consonancia con nuestra propia enmienda y con lo que ya hemos defendido y también votado en varias ocasiones en relación a este

legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi ley de seguridad privada ley del negocio privado una más con el objetivo de siempre que esta vez afecte al ámbito de la seguridad está entre la casualidad

una ley continuista en esa mentalidad impuesta por la ley de seguridad ciudadana esa que blinda y otorga todo tipo de prerrogativas

con cuerpos privados auxiliares la onu ya trató esta cuestión analizando por primera vez la cuestión de lascompañías de seguridad privada en el dos mil cinco desde el grupo de trabajo de naciones unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre autodeterminación fíjense

que le daba a esta cuestión imagínese el punto de arranque el enfoque que le daba las naciones unidas en este grupo de trabajo se subrayó

por el cual se hacían tres peticiones la primera elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para la regulación el seguimiento y la supervisión de las actividades de estas empresas de seguridad privada dos la obligación de formar al personal de las empresas de seguridad privada en derechos humanos

de monitoreo de las actividades de estas empresas reclamaciones bastante básicas bastante lógicas españa fue uno de los estados que se opuso y que votó en contra de este proyecto y

pretende dejar manos libres a estas empresas para actuar en materias de orden público empresas a las que aumentarán en prerrogativas en funciones y en contratos

con superpoblación policial como la nuestra quieren sacar también a la calle a los agentes de seguridad privada como si no fuera suficiente ya con los cuatro uniformes que estamos malamente acostumbrados a ver emplearán en ello a más efectivos cuando la lógica

los ratios de policía por kilómetro cuadrado o por habitante

aportados por la consejería nos indican que en este país sobran efectivos policiales

tiene repartidos en distintos departamentos un gasto de seguridad privada de más de diez millónes de euros tal vez el capítulo más sorprendente es ese que utiliza la ertzaintza es decir un servicio público de seguridad que contrata seguridad privada

de tres coma cinco millónes de euros un gasto que consideramos se debe reducir de ahí la enmienda que incluíamos una reivindicación que mantenemos señorías del pp con esta iniciativa privatizadora ustedes no dividirán sino multiplicarán

la educación de paso restan personal en los servicios públicos ahora ustedes no restarán efectivos de las fuerzas de seguridad sino que

eguerdi on guztioi en primer lugar hemos de poner de relieve que la actual ley de seguridad privada la ley veintitrés barra mil novecientos noventa y dos fue aprobada hace más de veinte años

con el objetivo de regular y poner orden en un sector incipiente

los presupuestos de tal regulación y la realidad en la que se fundaban han sido claramente superados a día de hoy por el creciente desarrollo de la seguridad privada

estamos hablando de un importante sector económico que factura anualmente más de tres mil doscientos millónes de euros y sus mil quinientos empresas emplean a casi noventa mil personas sektoreak

en el congreso y en el senado las cortes generales que es preciso un nuevo marco normativo

este sector de manera integral adaptándose tanto a las expectativas del sector económico implicado y de sus usuarios como a la realidad de distribución competencial entre el estado

y garantizando el respeto a todos los derechos fundamentales hemos de reconocer también

en el congreso mejora parcialmente la redacción de los borradores iniciales en el sentido competencial ya que incluso se mermaban sustancialmente competencias que la comunidad autónoma

en gran medida gracias al trabajo de nuestros compañeros y compañeras del grupo vasco en el congreso de los diputados a través de sus enmiendas en concreto cincuenta y seis

la salvaguarda de las competencias en lo referente a la seguridad privada

exactamente la misma posición en el mismo plano que al ministerio de interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado puesto que se reconocen las competencias del gobierno vasco

de determinación de los criterios generales de funcionamiento de formación de los agentes privados de seguridad de acreditación de sus competencias y destrezas de potestad sancionadora

en la comisión de interior del congreso el diecisiete de octubre del dos mil trece el partido nacionalista vasco votó a favor dando un margen de confianza a que la ley iba a ser sustancialmente mejorada en la tramitación del senado como así lo manifestó

en su comparecencia y entendiendo así que el proyecto de ley era sustancialmente mejorable nuestro grupo en el senado también presentó una batería de enmiendas en concreto treinta y cuatro que fueron rechazadas en su integridad estas enmiendas iban en un doble sentido en primer lugar con la clara intención de seguir profundizando

y también para lograr concretar cuál es el límite de actuación

partiendo del hecho de que en ningún caso los agentes privados de seguridad podrán realizar las funciones que corresponden únicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado os mossos de escuadra

interrogar patrullar en espacios públicos etcétera en este mismo sentido respecto al posicionamiento del departamento de seguridad del gobierno vasco como

de la señora consejera de fecha de trece de enero a consecuencia de sus preguntas como en la reciente comparecencia

en respuesta a su pregunta oral quedó claramente definido su posicionamiento al respecto y no voy a insistir en el mismo porque creo que lo tiene bastante claro como ha manifestado es por ello que aun compartiendo la necesidad de una nueva regulación en este sector dada

y también manifestando la satisfacción del grupo vasco con el ámbito competencial de esta norma que es una de las pocas leyes en esta legislatura que por cierto

casi escrupuloso en las competencias autonómicas en materia de seguridad

no obstante esto mencionado la filosofía de este proyecto de ley y el procedimiento seguido

del rodillo en el senado a las enmiendas presentadas por el grupo vasco hace que el grupo vasco

por eso también nosotros hemos conseguido y agradecemos al esfuerzo al señor unzalu y al señor arzuaga el firmar una transaccional en la cual ya no se puede instar a retirar el proyecto de ley pero sí

a dicha ley entendemos que se puede darse una peligrosa vinculación entre la ley de seguridad ciudadana recientemente rechazada por esta cámara y a la que se hacía mención

y la seguridad privada y puede darse un claro intento de expansión del derecho punitivo que

incluso contribuir a tratar de criminalizar como manifestamos el día que se trató el proyecto de seguridad ciudadana la criminalización de la contestación ciudadana que está viendo

ante reivindicaciones de derechos que están siendo vulnerados es por ello que hemos firmado la enmienda transaccional con el grupo socialista

manifestamos o recogemos lo que se recogía en la propuesta inicial y que también nuestra enmienda transaccional recogía

y por ello se rechaza el proyecto de seguridad privada aprobado hoy se sigue insistiendo en que se reconozca al gobierno vasco

seguir las mismas reglas de reparto competencial que en la seguridad pública en la seguridad privada

insta al gobierno vasco a defender en todos los ámbitos el carácter público de las políticas de seguridad incluso

de la seguridad privada o a expensas del servicio público

determinados servicios que no tengan por qué ser encomendados de ordinario la fuerza de seguridad desde la perspectiva del riesgo existente pero no compartimos el argumento de externalizar de un modo genérico los servicios encomendados a la seguridad pública

y solicitamos también a upyd que se sume a esta enmienda besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

de seguridad porque aquí por parte de algunos se ha hablado de muchas cosas menos de esta ley y de la seguridad

se aprobó en comisión de interior la ley de seguridad privada que después pasó al senado y que como ha dicho el señor unzalu hoy mismo ha sido en el congreso empezaré diciendo que la seguridad está consustancialmente unida con la libertad y que es necesario

ytambién un equilibrio razonable lo alcance el binomio seguridad pública seguridad privada

la seguridad privada es una submateria que se encaja dentro del concepto de seguridad pública debe ser una materia complementaria eso sí absolutamente subordinada como ha dicho el señor

la seguridad privada es un sector en el que rondan las mil quinientos empresas

en que no es una actividad marginal de nuestra economía y que por lo tanto exige una regulación adecuada

este momento era la ley de mil novecientos noventa y dos que vino a sustituir la dispersión normativa que hasta ese momento existía

muchas las lagunas jurídicas que han motivado que se tenga que ir completando a través de un profuso desarrollo reglamentario

nueva regulación que ya fue planteada por el señor rubalcaba pero que finalmente no se produjo es necesario por tanto una nueva reglamentación de la colaboración entre el sector público y el privado dirigido a una mayor eficiencia y eficacia en la respuesta a la necesidad de seguridad se trata

y la seguridad privada como dos compartimentos estancos y dejando siempre a salvo sí dejando siempre a salvo el monopolio del poder público sobre la seguridad

colaboración que se da en todos los gobiernos en este también no se trata de establecer un nuevo modelo sino poner al día el modelo

por ello la nueva normativa lo que pretende es modernizar y actualizar el marco legal

en la misma además de regular las actividades y servicios de seguridad privada se establece un marco de colaboración entre la seguridad privada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

por contra la formación de los mismos habrá un mayor control de las empresas se aumentarán las acciones a las que incumplan los deberes establecidos en la ley y no va a suponer

de policías o de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

ya desde el inicio del debate de esta ley se han ido introduciendo modificaciones primero en el congreso después en el senado dirigidas a mejorar la ley y adaptarla a la distribución competencial

en que supone una privatización de la seguridad en que solo aquellos que tengan medios o recursos económicos van a poder pagársela

en la propia presentación de la ley se dijo que nada más lejos de la realidad y hoy aquí también este grupo quiere dejarlo claro se trata de regular un modelo de seguridad privada auxiliar y subordinada a la seguridad pública señorías como decía antes se trata de regular de forma más completa y acorde con la situación actual la seguridad privada

en ningún caso supone la privatización de la seguridad eso supone una acusación de trazo

al que tan acostumbrados nos tienen algunos como ustedes pero que no se corresponde ni con la realidad ni con el contenido de la ley

en determinados supuestos y se va a hacer recogiendo una demanda de los trabajadores del sector y de sus sindicatos

de estas algunas de las partes del articulado que provocaron más recelos como la relativa

espacios ha quedado eliminadas de la ley también la posibilidad de que los vigilantes de seguridad puedan detener y retener ha sido limitada

en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y no hay que olvidar que este supuesto lo permite la ley de enjuiciamiento criminal para cualquier

persona que puede detener a un delincuente cuando intente perpetrar un delito o lo esté cometiendo

sus funciones fuera de los espacios habituales siempre y cuando sea autorizado por los órganos competentes

también ha sido modificado y así en la nueva redacción se establece que esa vigilancia solo podrá realizarse en parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados y cuando la vigilancia se realiza sobre polígonos industriales o en urbanizaciones privadas

siempre que no tengan la calificación de vía pública porque si tienen dicha calificación

también con relación a los datos de personas que retengan los podrán anotar pero no hacer averiguaciones al respecto

se han incorporado medio centenar de enmiendas y como usted decía hoy aquí en el congreso tendrá su aprobación definitiva he de decirles

ustedes señor unzalu no presentaron una enmienda a la totalidad no presentaron una enmienda a la totalidad porque consideraron conveniente que se debatiera parece que luego

en su labor de oposición y eso sí en el senado presentó el correspondiente veto

desde algunos ámbitos se duda de la constitucionalidad de la ley y usted señor unzalu en la proposición vuelve a introducir esas críticas y las ha hecho hoy aquí al margen de otras

y muchas han dejado de tener sentido muchas de las críticas que ustedes hacían han dejado de tener sentido porque el articulado se ha modificado se lo he dicho así el primer punto en su parte dispositiva no tiene sentido porque no hay una privatización la segunda tampoco porque el debate no se puede retirar el senado porque ya se ha producido

por ello lo que ustedes deberían haber hecho es retirar esta proposición no de ley no tiene ningún sentido ni virtualidad convertir este parlamento en la segunda instancia del congreso de los diputados

y día también no sé si porque allí consideran que no hacen suficiente oposición o porque la que hacen allí y entonces tienen que trasladar a otras cámaras la oposición que no hacen allí

torticera porque usted habla de la privatización de la seguridad me quiere usted decir que la seguridad de los cargos amenazados

o que la seguridad de las mujeres víctimas de malos tratos es menos seguridad y está privatizada porque no estaba directamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado me dice que es menos seguridad

en ese caso otros grupos como el partido nacionalista vasco señalaban cuando esto se planteó que era necesaria esta ley porque la anterior regulación era obsoleta

con relación a la enmienda no la entendemos muy bien porque cuando se producía ese debate en el congreso se apoyaba la ley y además en la comparecencia que el grupo nacionalista vasco en el congreso hizo después

era porque respetaba las competencias en la materia las competencias de las comunidades autónomas lo tengo ahí era una de las comunicaciones que hizo el grupo parlamentario

olabarria señalaba que con esta ley nos hemos aproximado a un buen equilibrio entre la seguridad pública y seguridad privada o que se ha acertado con esta ley o que se reconoce que esta ley ha habido una flexibilidad y un respeto competencial que no existió en el año mil novecientos noventa y dos y añadía que había que valorar muy positivamente el proyecto de ley que se había elaborado y le decía que es difícil de entender porque claro luego el señor anasagasti señalaba

claro que en el congreso lo califiquen como una muy buena ley y muy positivamente este proyecto de ley y en el senado se diga pues que es un debate caduco y absurdo pues no lo acabamos de entender no sabemos si es que también da vértigo no hacer oposición y entonces

allí a hoy están votando que no fundamentalmente porque además dicen que hay un exceso de seguridad y aquí han presentado la enmienda que tampoco entendemos con relación a bildu

determinados uniformes los de negro y con capucha sí pero otros parecen que no les gustan yo ya les digo en resumen

no tenía sentido ha dejado de tenerlo aún más todavía y la enmienda tampoco tiene ningún sentido como les decía el único sentido es intentar convertir este parlamento en la segunda instancia del congreso de los diputados porque allí o no saben hacer oposición o no lo hacen suficientemente bien nada más muchas gracias

es una preocupación una preocupación que tenemos los socialistas vascos los socialistas españoles y los socialistas de cualquier otra comunidad autónoma y es la política que están haciendo ustedes con respecto a todo lo que tiene que ver con lo público

para restringir lo público e incrementar lo privado eso es lo que nos preocupa y por eso lo hemos traído aquí

esto es un ejemplo más uno pero hay muchos más como le he dicho en mi primera intervención de una política deliberada de una política de una cruzada diría yo de una cruzada del gobierno del pp para restringir lo público

y esto es un ejemplo clarísimo mire usted puede dar vueltas a lo que quiera pero el principio de complementariedad es muy claro complementar quiere decir que de un todo en este caso la seguridad privada hay acciones que se complementan entre ellas es decir pone la complementariedad es que no se cubre desde lo público porque dejamos paso a lo privado esto es así quiera usted como no y mire lo que dice el artículo uno el artículo cuatro usted ha dicho aquí

habiendo en el articulado siguen desarrollándose en el articulado los mismos principios de complementariedad que desde nuestro punto de vista es romper

y la privatización es decir dar negocio esas dos cuestiones se siguen manteniendo en el artículo uno en el artículo cuatro en el artículo cinco en el artículo quince

que habla de la vigilancia perimetral de los espacios penitenciarios

ustedes lo siguen incorporando la posibilidad de que la seguridad privada que

experiencia piloto ustedes han hecho una cosa el gobierno del pp ha hecho una cosa hacer un concurso y han adjudicado a una ute han adjudicado a una ute la seguridad de estos recintos por siete millónes trescientos noventa y uno mil euros lo que ha supuesto un coste de

por cada trabajador de estas empresas de esta ute de empresas privadas

cuáles son los salarios que se perciben en estas empresas de seguridad de los más bajos ahora eso sí la rentabilidad los beneficios de las empresas de seguridad son de los más altos de cualquier empresa de este país eso es lo que han hecho ustedes

no puede el estamento público hacer esa seguridad cincuenta y ocho mil por cada persona por cada trabajador que va dentro

con las empresas de seguridad esto es así y en cuanto a lo que usted me dice sobre referencias de ultravigilancia nosotros si se lee bien si se lee usted bien

la que nosotros hacíamos efectivamente cuando nuestro grupo preparó esta proposición no de ley todavía no había pasado al senado y por eso hacíamos esto pero hoy lo que aquí prevalece es la enmienda transaccional en la que dice que no queremos expandir la privatización por supuesto que somos conscientes que a partir de la ley de mil novecientos noventa y dos una privatización de ciertos servicios lo que ocurre que siempre y en aquella ley se dejaba bien claro que era supeditado a la seguridad pública y no como aquí dicen ustedes en este proyecto de ley que es complementario la seguridad privada de la seguridad pública esas son las cuestiones

es donde ustedes meten la privatización y donde meten el negocio muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna mistoak ez du hitzik hartu behar

es que aquí se está instituyendo a unas empresas concretas para que puedan ser autoridades de detención es una atribución

a las cuales se les está dando nichos se les está dando espacios que hasta ahora al servicio público de seguridad

según las tasas según los datos de delitos y de faltas el influir en este ámbito era importante porque es un nicho de empleo es un nicho de negocio usted misma señora llanos dice que hay no sé cuántas empresas y a las cuales hay que darles una solución para qué porque es un

de primer orden de primera necesidad consideramos que con esta ley se están realizando dos privatizaciones en una primero se está

se está privatizando el espacio público unas atribuciones a unas empresas que además

absolutamente inmanejable con ramificaciones en multinacionales

de las vinculaciones que tienen con sectores de extrema derecha

valorando al margen del crecimiento del sector la posibilidad de generar empleo más

real de necesidades de seguridad nuevamente consideramos que se está jugando con un peligroso concepto de seguridad percibida

injustificables sentimientos de inseguridad o de alarma que puede haber o tal vez no en la ciudadanía y esta vez para hacer negocio negocio vinculado además a intereses muy próximos de los proponentes de esta ley en cortes generales nuevamente

se utiliza como palanca para recortar derechos

bai eskerrik asko no tenía intención de replicar pero bueno dado que ha habido alguna alusión pues me veo obligado a ello bueno respecto a lo que decía la señora llanos de nuestro posicionamiento bueno creo que

tanto aquí como en las cortes aún compartiendo y lo seguimos compartiendo la necesidad de una nueva regulación en esta materia

y aún considerando que en esta materia el reparto se ha respetado el reparto competencial

entendemos que el espíritu de la ley pues no es adecuado y por eso nuestro posicionamiento es el que ha sido ha sido negativo hoy en el congreso y hoy también

criticaba sutilmente la variación de posicionamiento del partido nacionalista vasco que los representantes del partido nacionalista vasco

lo que crean más importante interesante para la comunidad autónoma de euskadi y para los ciudadanos y ciudadanas que la integran y respecto a la enmienda de totalidad que

yo creo que es muy clara el primer punto es exactamente el que se recoge en la transaccional las políticas de seguridad deben

y lo que se pedía como mejora respecto a la tramitación que se estaba haciendo era que se refuerce el carácter público de dichas políticas con dos aspectos concretos que estaban un poco

y los espacios donde pueden prestar servicio de modo que no se confundan con las atribuciones policiales y se impide la externalización expansiva de la seguridad privada a expensa del servicio público yo creo que está bastante claro y el segundo punto

en la defensa de nuestro ámbito competencial finalmente

rechaza pero no se rechaza que hay que hacer de la necesidad virtud yo creo

hemos dicho que rechazamos hoy en madrid este proyecto de ley lo décimos aquí también que lo rechazamos y

yo creo que hay que ser consecuente con los planteamientos y ese es el planteamiento que hoy traemos aquí

respecto al segundo punto que no entendía o que no compartía plenamente de la enmienda transaccional que son empresas yo creo que hemos dejado constancia aquí de que es un sector económico importante

y es evidente que requiere de una regulación y más en la situación económica actual en la que vivimos

respecto a la privatización creo que aquí se ha hablado del binomio seguridad libertad

digo porque en las enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos de dos mil catorce

en un área que me tocó llevar a mí administración pública y justicia

de las partidas para la vigilancia y seguridad en los palacios de justicia y en los centros de menores eso no se correspondía

de seguridad en las partidas de la ertzaintza sino más bien con enmiendas de reducción

de la necesidad hay que hacer virtud y yo no sé en las instituciones donde gobierna bildu

de esos edificios institucionales si se presta por

por el final usted hablaba señor zorrilla de los principios

y yo no tengo por menos mire yo es que realmente parte de la argumentación que el señor olabarria dio yo la comparto totalmente hablaba

que se apuntan principios como el de subsidiariedad e importancia conceptual para el desempeño de funciones que le correspondan

esto es lo que dicen las empresas que configuran el sector y sus organizaciones sindicales y no será mi grupo el que refute estas opiniones

si se lo he dicho la modificación era necesaria y el propio

a modificar pero claro ya sabemos que los socialistas anunciaban muchas cosas que luego nunca

y la necesidad venía demanda por los cambios tecnológicos por la existencia de nuevos riesgos y amenazas por cambios normativos

que provocaba situaciones de desprotección jurídica de la personas que trabajaban en este sector existían situaciones señor unzalu como la de los escoltas privados aquellas personas que estaban

las personas que estaban llevando a cabo vigilancias fuera de un recinto cerrado

que no tenían regulación que no se trata de dar se trata de dar regulación de dar más regulación al sector y que si el sector está regulado

que la ley de la selva y la ley del más fuerte es lo que más le gusta pero de lo que se trata es de que esté reglamentado jurídicamente y es más el propio señor olabarria le decía señor que no habían introducido ninguna enmienda solicitando la modificación con respecto a aquellos términos de la ley que no le gustaban que usted ha dicho aquí

pero si es que ustedes solo hacen críticas de trazo grueso pero si es que usted viene aquí a decir en lo público pero qué me está contando lo público ustedes donde gobiernan o cuando han gobernado en este mismo gobierno lo han publificado todo no no

haciendo gestión indirecta de servicios públicos o es que han contratado funcionarios para todos los servicios públicos qué pasa que si los servicios privados

sigue siendo un servicio público siempre y cuando el que esté al mando sea el partido socialista pero si el que está en un gobierno

y presta un servicio público a través de una gestión indirecta no es socialista entonces hay una privatización entonces hay una privatización porque no me ha contestado qué pasa que está privatizada la protección

estaba privatiza la protección de las mujeres víctimas de malos tratos o seguía siendo un servicio público a pesar de que estuviese

por personal que no era fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o qué es privatización privatización es lo que dice el partido socialista que es privatización y el resto

habla de complementariedad que le he dicho yo complementariedad y subordinación no va a perder el carácter público la seguridad que no

es complementar la seguridad pública igual que se ha venido haciendo pero ahora de manera regulada establecida una serie de requisitos legales y por cierto no han sido el rodillo ciu estaba de acuerdo y ustedes el partido nacionalista vasco en un principio también luego ya les he dicho les ha dado vértigo por lo visto

que esto no nos conviene pero estaban de acuerdo con la ley en un principio

una de las cosas que ponían en valor era precisamente el de una vez por todas actualizar una ley regular un sector que estaba desregulado y que se habían observado

autonómicas y mire sabe lo que más me sorprende señor unzalu que usted firme una enmienda hablando de seguridad con quien no cree

punto uno y punto tres separados si pudiera ser punto uno y punto tres arazorik puntuka bozkatzeko